hace unas semanas dos noticias hacían que aumentase la preocupación ante una posible reapertura por un lado se nos anunciaba que se habían finalizado las obras en la vasija del reactor

para la renovación de la licencia las obras en la vasija

que por cierto no han cumplido con dichos veintidós requisitos ni tan siquiera con los que se les exigía en el año dos mil nueve así en la nota de la reunión del comité de gestión

aquellos aspectos que se consideren necesarios desde un punto de vista regulador y que no hayan sido debidamente satisfechos por el titular deberán recogerse como condición dando por cerrada la evaluación es decir el consejo de seguridad nuclear

dice que lo que antes eran requisitos obligatorios ante una posible reapertura

dando por cerrada la evaluación de una manera positiva para nuclenor así que las cosas claras segurtasun nuklearraren batzordearen helburu bakarra

berotzen jarraitzea da beti ere kontsumitzaileen kalterako el único objetivo del csn es asegurar que el dinero siga fluyendo desde las cuentas de los y las consumidoras

y es que de alguna manera hay que pagar los servicios políticos prestados a tanto

en los consejos de dirección de dichas empresas y ganar millónes de euros como

a sus políticas por otro lado tras conocer la noticia sobre

ya se le había dado la valoración positiva para la reapertura con los votos favorables de los representantes del partido popular y uno del partido socialista

la otra representante del partido socialista obrero español votó en contra ante este panorama la diputación de araba que por lo que se ve tiene mucha mayor sensibilidad ante los temas de salud y seguridad que este gobierno en nombre del diputado de medio ambiente y urbanismo josean galera decía lo siguiente que no se quedarían de manos cruzadas

este gobierno callaba el señor galera también decía lo siguiente recurriría la decisión de emitir declaración de impacto ambiental favorable

este gobierno que recordemos que cuenta con un representante en el consejo asesor del csn

sí lo hizo pero no hizo nada ante todo lo que estaba sucediendo el señor galera al que se le ve por lo menos en el tema nuclear una persona cabal hablaba en estos términos en relación al almacenamiento nuclear ante una posible contaminación este tipo de sustancias no entienden de fronteras administrativas

seguía diciendo hablamos de un lugar en el que sus aguas subterráneas están conectadas con el gran embalse subterráneo que tenemos lautada espero que esa sensibilidad de no envenenar nuestras aguas y a los alaveses lo tenga también en el tema del fracking pero por lo menos ante uno de los riesgos

no sé yo hay que ser conscientes de que el almacén temporal de residuos radiactivos es algo indispensable para el propio desmantelamiento definitivo pero hoy por hoy

a la reapertura de garoña y no nos engañemos ni engañemos al pueblo de araba lo único de lo que deberíamos estar hablando hoy aquí es de cómo deberían ir

que nadie pretenda crear falsos debates ante un consenso existente ya en araba y en esta cámara la calle ha reclamado reclama

que pongamos todos los medios políticos al servicio del desmantelamiento definitivo pero sin embargo el poder de las energéticas es tanto y su sombra

hemos avanzado más hacia la reapertura que hacia el desmantelamiento y los responsables tienen nombres y apellidos y tienen siglas políticas todo ha pasado y pasa por la nula voluntad política que ha existido desde todos españoles para cerrar garoña una vez más queda de manifiesto qué es lo que podemos esperar del gobierno español de cualquiera de ellos la más absoluta falta de respeto institucional e imposición en lo político

no cabe acuerdo ni pacto con quien un día sí y otro también

al respeto espainiatik datozen inposaketen

es un ejemplo más de la imposición española un ejemplo más de que debemos conquistar espacios soberanos que nos permitan definir una política energética propia

energéticas y centrada en las necesidades sociales y estratégicas que tenemos como país mientras esto no sea así absolutamente nada

pues como alguno de ustedes sabrán tras el visto bueno del pasado cuatro de noviembre emanado por el csn

tenemos dos meses para poder presentar recurso contencioso administrativo ante la declaración de impacto ambiental por no haber tenido en cuenta e euskadi como afectado por la posible reapertura de la central por ello al consenso político que ya existía en esta cámara a la que se sumó incluso el partido popular

la reapertura y así dar pasos firmes hacia el desmantelamiento definitivo nadie puede decir hoy

ante las mismas circunstancias que la última vez porque no es cierto nadie puede negar las prisas de nuclenor para cerrar el tema de garoña antes del veinte de diciembre aunque como ya he dicho antes todos los gobiernos que han pasado por la moncloa han defendido los intereses de las energéticas por lo menos hasta ahora

señalaba en uno de sus artículos y decía no hay duda de que garoña ha completado su ciclo económico es decir sus costes de inversión están recuperados desde la aprobación en mil novecientos noventa y siete de la ley del sector eléctrico sus propietarios han recibido los ctc

a sus costes variables la prolongación de la vida útil de garoña no haría sino seguir aumentando sus beneficios supranormales

y los precios de la electricidad continuaba diciendo los altos beneficios de garoña no provienen del acierto o el mayor riesgo asumido por sus propietarios porque garoña fue construida bajo un modelo regulatorio que garantizaba su rentabilidad esta garantía se extendió más tarde a través de los ctc que garoña percibió como parte del conjunto de centrales sujetas

creo que todo está claro la energía nuclear no abarata los costes ni beneficia a la ciudadanía únicamente favorece a las empresas

eso se llaman puertas giratorias y quienes no apoyan los intereses de la ciudadanía en las instituciones y premian los intereses de las empresas son cómplices y responsables

enpresa horietako administrazio kontseiluan bukatzen dutenentzako pero como por lo menos en esta cámara los consensos son más amplios y nadie

paso a explicarles la enmienda consensuada con el grupo nacionalistas vascos y socialistas de euskadi el primero de los puntos de la enmienda transaccionada es

recurso contra la declaración de impacto medioambiental que autoriza la instalación temporal de un almacén de material nuclear en la central nuclear de garoña el segundo punto

ante las instituciones vascas que no han recibido información ni consulta alguna al respecto tercero de los puntos el parlamento vasco insta al gobierno de españa en coherencia con los reiterativos pronunciamientos de las instituciones vascas y especialmente las alavesas

a no autorizar una nueva licencia para la reapertura de estas instalaciones

el parlamento vasco solicitará el amparo de la comisión europea

para que supervise el procedimiento de concesión de una hipotética licencia de apertura de la central de garoña y para que se asegure del cumplimiento de las exigencias de seguridad

ante la posibilidad de concesión de una nueva licencia parlamento vasco

de participar en la comisión interinstitucional para el seguimiento del proceso de desmantelamiento de la central nuclear de garoña acordada por las juntas generales de araba en este sentido insta a la diputación foral y las juntas generales de araba

comisión que recordemos no solo debe ser política sino social también ya que así se acordó en dichas juntas gaur

zerbaitetarako balio duela hoy volvemos a ponernos ante un espejo hoy volvemos

cada uno en esta cámara hoy podemos demostrar a la ciudadanía que desde la política se pueden cambiar las cosas y defender los legítimos intereses de la población

hoy no solo araba está pendiente de lo que vote cada uno de los partidos aquí representados hoy toda la población vasca lo está

un consenso amplio al respecto en la defensa del desmantelamiento definitivo de la central nuclear de garoña besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lópez de munain jauna

creo que tratamos en este punto diversos temas que están todos ellos perfectamente relacionados y que podríamos diferenciar

por un lado la energía nuclear por otro lado la central nuclear de santa maría de garoña y finalmente la instalación o no

de un almacén temporal nuclear de todo ello y del proceder del gobierno de españa en todas estas cuestiones durante los últimos tiempos

la consejera tapia que en el actual mix energético la energía nuclear juega un papel importante y que sigue siendo por tanto necesaria que en el futuro ya se verá pero que a día de hoy la energía nuclear es necesaria

necesita una potencia garantizada de base que permita compensar los altibajos de precios y de potencia de las renovables también los picos y los valles de la demanda o los fallos de otras fuentes y ahí las nucleares cumplen su función

que contaminan la atmosfera y dependen de hidrocarburos o carbón importado por eso a nosotros nos parece bien conservar

siempre y cuando evidentemente cumplan todas las condiciones

que es algo que venimos exigiendo durante los últimos años la energía nuclear tiene aspectos positivos y tiene también aspectos negativos por otro lado

positivos de la energía nuclear es una energía barata o más barata que otras es una energía limpia o más limpia que otras

en este caso como las renovables y es una fuente de energía que no contribuye significativamente al cambio climático o que contribuye menos que otras fuentes de energía

es una energía que en general está mal vista es decir tiene mala prensa por así decirlo hay una sensibilidad social relevante en torno a ella

cuando las centrales nucleares no cumplen todos los requisitos técnicos necesarios y por otro lado y como otro aspecto negativo el almacenamiento de los residuos nucleares es complejo y dificultoso por tanto como todas las fuentes de energía tiene pros y contras y creo que

en esto deberíamos estar de acuerdo por esto nosotros hemos venido defendiendo que la central nuclear de garoña cumpliendo rigurosamente todos los requisitos exigidos y todas las condiciones de seguridad que sean necesarias

seguir funcionando y que no puede seguir funcionando si no cumple todos los requisitos técnicos insisto si no cumple todos los requisitos técnicos

ni esta central nuclear ni cualquier otra otro asunto si hablamos de en concreto la central nuclear de santa maría de garoña es una central que lleva parada

es una central nuclear que lleva parada tres años como consecuencia tal y como lo reconoció aquí la consejera del gobierno vasco lleva parada por razones

económicas es una central nuclear que tiene más de cuarenta años es una central nuclear que ha tenido en los últimos tiempos ciertos problemas técnicos

la renovación la llevaría a una vida útil de más de cuarenta años por otro lado hay una oposición social en euskadi y especialmente

al mantenimiento de esta central nuclear y esto evidentemente hay que decirlo y hay que reconocerlo y existe también una oposición institucional además de todo esto durante los últimos tiempos como consecuencia de determinadas decisiones del gobierno de españa

evidentemente mucha opacidad muchos tejemanejes ha habido mucho oscurantismo y en su momento se creó normativa ad hoc siendo esto así

debemos ser muy exigentes con el gobierno de españa en relación a las decisiones que se toma en relación a esta central nuclear todo ello hace que

y que exijamos que se actúe y que el gobierno de españa actúe con rigor y transparencia y también evidentemente con prudencia debidamente todas las decisiones que se toman por lo tanto en este punto comparto con el resto de grupos que efectivamente se exija al gobierno de españa todo el rigor y toda la transparencia en relación

nuclear si tenemos energía nuclear y tenemos centrales nucleares necesitamos disponer de un almacén nuclear o alquilarlo en el extranjero y pagar por ello precios muy elevados por ello

perfectamente compartir si existe energía nuclear hace falta un almacén nuclear digo por ser coherentes por no utilizar la demagogia

esto creo que es también perfectamente claro el pasado nueve de octubre el boletín oficial del estado publicó el estudio del impacto ambiental favorable a un almacén temporal

en la central se llevó a cabo en nuestra opinión de manera poco transparente y sin consultar o informar a las instituciones vascas

un nuevo error en el proceder opaco del gobierno de españa y esta forma de proceder del gobierno de españa en relación a esta cuestión durante los últimos años

en una máquina de hacer ciudadanos antinucleares o antinuclearistas en lugar de argumentar en lugar de explicar en lugar de actuar con la máxima transparencia

es muy negativo teniendo en cuenta todo eso presentamos esta enmienda de totalidad qué es lo que proponemos proponemos que este parlamento inste al gobierno de españa

todas las inversiones necesarias para que la central nuclear de santa maría de garoña pudiera si fuera el caso reiniciar su actividad respetando y haciendo respetar

toda la normativa europea de seguridad todos los requisitos técnicos y todas las exigencias internacionales sin ningún tipo de excepción

a los partidos políticos y a la sociedad de cuantos hechos y decisiones sean relevantes es decir exigimos también en este punto el máximo rigor

y en el segundo punto proponemos que este parlamento inste al gobierno de españa a mantener un diálogo fluido con el gobierno vasco y a informar a las instituciones vascas concernidas

y de todas las decisiones que se tomen en relación al futuro inmediato de la central nuclear de santa maría de garoña y a la posible instalación en ese mismo lugar de un almacén nuclear habida cuenta tanto la posición política de las instituciones vascas contrarias efectivamente

nuclear de garoña como también las propias características de la central nuclear y la sensibilidad social existente especialmente en el territorio histórico creo que es una enmienda exigente con el gobierno de españa creo que es una enmienda coherente y creo que es perfectamente razonable creo que es perfectamente defendible al menos por algunos otros grupos de esta cámara en relación a la transaccional y ya termino evidentemente no sorprende nada de lo que ahí aparece es básicamente lo que ustedes han defendido en los últimos tiempos mantiene esa misma línea yo en todo caso quiero preguntarles puesto que ustedes introducen ahí cinco

amplios y tocan distintos temas todos ellos muy interesantes por qué no exigen todos ustedes que el consejo de seguridad nuclear

de los partidos políticos por qué no exigen que el consejo de seguridad nuclear sea profesionalizado puesto que ustedes lo ponen en cuestión seguramente con razón

europea creo que podría haber sido un punto interesante que ustedes incluso aquellos partidos políticos que están dentro de ese consejo

su despolitización podrían hacerlo y no lo hacen pero quizá en su turno de palabra puedan explicarme

adelante porque en todo su argumentario se deja caer ya digo que seguramente con razón que el consejo de seguridad nuclear no es un consejo del que nos podamos fiar y que está politizado y que está tomado por partidos políticos como el pp

exijan su descolonización su profesionalización de esa forma yo creo que su enmienda transaccional sería mucho más completa gracias

sí gracias presidenta y buenos días a todos la central nuclear de garoña es un clásico en este parlamento

aquí en el parlamento vasco y en el resto de las instituciones vascas fundamentalmente en las alavesas en esta ocasión

en esta ocasión con un nuevo elemento la posibilidad de instalar temporalmente un almacén nuclear

cuando más pasos se dieron en el camino del cierre de la central pero con el último gobierno del partido popular el gobierno de rajoy la situación lejos de zanjarse ha terminado de dar la vuelta

la posibilidad de instalarlo temporalmente y por si todavía a alguien le queda alguna duda aunque lo dudo los socialistas queremos dejar claro nuestro compromiso

ni servirá de almacén nuclear un compromiso para la presente y para las futuras legislaturas

en el cierre de la central la única vez que se paró y antes ahora y después defenderemos la misma posición en enero del año pasado comenzó el proyecto del partido popular

desoyendo la opinión de las organizaciones que trabajan en materias medioambientales y olvidando la necesidad de afrontar un debate energético para el futuro que vaya más allá de los discursos

puedan por fin desarrollarse al ritmo que es necesario desarrollarse al ritmo demandado para poder dar respuesta a las necesidades de una sociedad como la nuestra mientras los gobiernos progresistas invierten desarrollan investigan y estudian el futuro de la energía limpia y de futuro el partido popular se plantea reabrir debates del pasado con centrales nucleares

a principios de este año mi grupo presentó una iniciativa urgente para impugnar esta decisión administrativa y expresar el rechazo a todo el procedimiento iniciado por el gobierno de rajoy

lo apoyamos todos los parlamentarios socialistas todos los del partido nacionalista vasco todos los de eh bildu y uno del partido popular parece que hoy no va a ser así seguramente no habrá votos díscolos quien dijo que iba a ser coherente y defender donde estuviera lo que piensa al respecto parece que no ha tenido éxito y esa proclamada influencia de los vascos en la dirección del partido popular nacional

el gobierno de rajoy por mucho que haya cambiado actitudes por motivos ajenos a su propia agenda sigue practicando lo que sabe de política confundir mayoría absoluta con poder absoluto confundir intereses de empresas con intereses de los ciudadanos en el expediente de esta central nuclear hay hechos reseñables que tienen lugar en los últimos años

el pp se reafirma en su intención de prórroga hasta el dos mil diecinueve

dos meses para solicitar la prórroga por cierto dos meses que la central deja pasar de largo esperando que se pase la incertidumbre regulatoria del sector en agosto del dos mil doce llega la reforma energética del gobierno de rajoy

para poder justificar la continuidad de la central y parece que de dinero no quieren hablar en diciembre del dos mil doce nuclenor decide el cese definitivo dejando un resquicio

en mayo del dos mil trece la central pide una prórroga de un año que le es concedida

considera que la situación económica prima sobre la de seguridad y confirma el cierre como queda claro los socialistas consideramos que existe un mercadeo poco serio entre el consejo de seguridad nuclear

practicando un pulso de beneficios económicos y posibles contrapartidas dejando al margen cuestiones básicas como la seguridad la transparencia y la participación en la toma de decisiones sorprende que en un momento en el que el debate energético lleva una dirección absolutamente contraria en el que la mayoría de los partidos políticos y una mayoría ciudadana se plantean un desarrollo energético de futuro

menos limpia más cara y desde luego más insegura por eso consideramos necesario un pacto de estado en materia de energía que convendría empezáramos a practicarlo en esta comunidad autónoma

es fundamental para garantizar el desarrollo de las energías renovables incluyendo el final de la energía nuclear en españa con este escenario en el que parecía más que evidente la improbable innecesaria e injustificada prorrogar a garoña

de la mayoría de los partidos políticos con una sociedad vasca alavesa y vitoriana

ahí está la posición del partido popular vasco y de españa pero ante unas elecciones generales en las que algunos lo quieren dejar todo atado y bien atado se reúne el consejo de seguridad nuclear

respuestas que la lógica no debieran de tener preguntas y una voz rompe la unanimidad de ese consejo con un voto particular justificado y más que argumentado

y en vez de valorar el contenido del voto se descalifica la falta de uniformidad que no de unidad confundiendo el consejo de seguridad nuclear con otra cosa

no cambie sus prácticas regulatorias y mantenga el periodo máximo de diez años para la eventual renovación de la central de garoña

una central nuclear solicita una autorización por un periodo superior a diez años y por primera vez una central pide prolongar su actividad hasta los sesenta años

que tanto la empresa como la opinión pública conozcan desde el primer momento el horizonte temporal con el que el consejo de seguridad nuclear

el cumplimiento de los requisitos exigidos algo que de momento todos desconocemos todas las centrales nucleares españolas se diseñaron para una vida útil de cuarenta años

cuarenta y tres y la lista de requisitos formulada por el csn para evaluar su renovación refleja sus importantes deficiencias que hasta ahora nadie cuestionaba narbona pide la máxima transparencia y participación pública en el proceso de evaluación de la solicitud de nuclenor

así como la recién aprobada directiva sobre seguridad nuclear

conocemos el contenido de la explicación de quien se opone a la unanimidad del consejo de seguridad nuclear conocemos lo que parece que pretende el gobierno de españa

ha salido a la calle para expresarse y decir que está en contra de la reapertura conocemos a políticos que un día de una forma díscola votan una cosa

dicen otra conocemos la necesidad de invertir en el sentido amplio de la palabra en la profundización y desarrollo de las energías renovables

conocemos la posibilidad de seguir teniendo energía sin garoña la responsabilidad de un gobierno es que sus ciudadanos puedan tener energía

sigan teniendo servicios y conocemos la negativa política y ciudadana a un cementerio nuclear y lo peor de todo conocemos a un partido popular que conociendo todo

prefiere seguir haciendo guiños a empresas ahogando a los inversores de las renovables negando el cambio climático y empeñándose en mantener la energía nuclear mientras pueda a pesar de todo y de todos hoy este parlamento volverá a posicionarse en contra de los posicionamientos del partido popular tal y como quedan las firmas de la enmienda transaccional volveremos a ser una amplia mayoría

y de construir un error tan grande como la reapertura de garoña

esperemos no tener que oír en esta tribuna discursos aprovechando la campaña electoral que en el momento que unos gobiernan va en contra de lo dicho porque los discursos lo aguantan todo pero a los ciudadanos

de garoña en este parlamento y ha tenido tres fases la primera hace cuatro años cuando pedíamos el cierre de la central

de la central pedimos evidentemente el desmantelamiento para que se evitaran futuras tentaciones de reapertura y hoy estamos aquí no porque toque hablar de garoña sino porque nos ha movilizado el último comunicado del consejo de seguridad nuclear y tenemos que protestar frente a ese comunicado en dos formas en la forma y en el fondo en la forma porque evidentemente nos hemos enterado por la prensa y porque no ha habido una comunicación

ni a los ayuntamientos afectados ni tampoco al gobierno vasco entendemos que en este tema

fronteras físicas y creemos que tanto los ciudadanos de álava

de lo acontecido desde el punto de vista del fondo tenemos la sensación

las gentes habitualmente mejor informadas incluso hacen apuestas ya de que el gobierno en funciones del pp

va a autorizar a nuclenor a que reabra garoña y por qué porque

y para utilizarlo evidentemente tiene que poner en marcha otra vez la empresa nuclear para que esta produzca desechos y vayan a ese almacén

en el fondo de una forma encubierta está también reconociendo que luego le va a dar autorización para que empiece a funcionar porque si no le diera autorización para reabrir la central tampoco le hubiera dado por pura lógica una autorización previa para que instalara un almacén nuclear almacén que evidentemente

si algún día empieza a funcionar la central nuclear de garoña por todo esto tenemos la

de que hay una trama para poner en marcha garoña o para que el permiso de poner en marcha garoña llegue antes de las elecciones yo no voy a hablar de tarifas eléctricas no voy a hablar de electricidad porque evidentemente los últimos tres años sin que haya funcionado garoña

y que se puede vivir muy bien sin garoña y que la electricidad no ha subido y si ha subido no ha sido por el efecto de garoña yo voy a hablar solamente de seguridad

transaccional los cinco puntos solo hablan de la central nuclear de garoña eso no es hablar

obsoleta vieja y cuyo principal peligro es la seguridad nosotros entendemos que el beneficio de una empresa y el posterior reparto de los dividendos a los accionistas es uno de los motores

justo o injusto mejor o peor pero es sistema que en el occidente de europa nos hemos autoregalado pero sí habría que recordar desde un punto de vista ético

tiene que tener algún freno no se puede permitir una actividad empresarial cuando el dividendo a repartir se basa en el peligro de

de la central también habría que dar un toque de atención a esta ambición o a esta codicia de beneficios porque pueden tener o pueden estar sufragados con el riesgo de decenas de miles de personas que habitan cerca dela central

tendría algo así como cincuenta y cinco años de funcionamiento se quiere ampliar el cuarenta por ciento más

en cincuenta y cinco y lo que se ha estado haciendo hasta ahora ha sido evidentemente un recauchutado de la central

en verano pues que hay unos baches que en lugar de arreglarse todo el firme de la carretera

y sabemos que dentro de cuatro meses va a haber otra vez otro bache pero es una medida

con una central nuclear la misma empresa reconoció que la vasija tenía fisuras

pepe gotera y otilio con pegamento imedio sino que se habrá utilizado

se está tapando una fisura de un hormigón que lleva cincuenta años ya allí y que esa fisura si algún día ese recauchutado de la vasija se vuelve a reblandecer y hay otra fisura por ahí no va a aparecer no se va a escapar ni vapor de agua

con la naturaleza con la atmósfera va a ser completamente incontrolable por la mano del hombre y va a depender simplemente de la voluntad de la dirección y de la velocidad del viento muchas veces hay que visualizar la antigüedad de las instalaciones y yo como puede que cuarenta años haya gente el tiempo es relativo y puede que cuarenta años le parezcan a una persona poco mucho

y el ejemplo es en qué se parecen el seat ochocientos cincuenta con la central nuclear de garoña

ahora no pasaría ni la más generosa de las itv no estaría homologado en ningún país del mundo y sin embargo fue un coche que se usó qué relación tiene con garoña pues que son del mismo año y así como nosotros no montaríamos en un ochocientos cincuenta no sé por qué tenemos que fiarnos de una central nuclear que nació

y la central nuclear de garoña empezó a construirse en el año mil novecientos sesenta y seis aunque posteriormente se inaugurara en año mil novecientos setenta y hablando de seguridad pues también yo creo que hablar de una cosa que todavía nadie ha dicho porque me parece importante

a hablarnos del futuro a pintarnos un hipotético

porque tristemente hemos tenido que sean conocidas tres ocasiones que se llaman harrisburg chernobyl

pero no fueron por el accidente nuclear fueron por el tsunami el accidente nuclear

porque en primer lugar estaban casi todos muertos por el tsunami previo y porque el tsunami dio tiempo a la evacuación

pensar lo que tenemos las decenas de miles de personas que vivimos en un perímetro

siguen viviendo fuera de sus pueblos de hecho hace mes y medio el gobierno japonés dio

volver a vivir ahí y los cálculos son que hasta dos mil diecisiete es decir seis años y medio después del accidente nuclear

la empresa propietaria de fukushima ha reconocido que tardará cuarenta años

ningún tipo de escape yo creo que nadie quiere eso para los ayuntamientos alaveses del sur

que solo con visualizar lo que ocurrió en fukushima es que hay otros elementos que ya no tienen que entrar ya no se puede hablar

tenemos que hablar de la seguridad y la seguridad evidentemente

por una serie de medidas la primera es esa que la central se hizo para cuarenta años

no se puede ampliar durante un cuarenta por ciento más hasta los cincuenta y cinco yo creo que la votación está clara y quiero recordar lo que he dicho al principio

a mí no me cabe absolutamente ninguna duda de que el posicionamiento del gobierno vasco del lehendakari urkullu siempre ha sido clarísimo a favor en primer lugar del cierre de garoña y en segundo lugar del desmantelamiento de la misma espero que hoy tengamos una mayoría como la que tuvimos hace meses

muchas gracias presidenta buenos días señoras y señores parlamentarios bien estamos a un mes de las elecciones y

dar caña con garoña al gobierno central en periodo preelectoral pues bueno vamos a entender que es un poco lo que suele pasar yo voy a eludir

nuclear y me voy a centrar en el texto y en lo pedido en la iniciativa por enésima vez y en las mismas claves hoy volvemos a debatir sobre la central nuclear de santa maría de garoña sobre su continuidad como empresa de

hemos debatido en los últimos tiempos en el parlamento vasco pues bueno bien es la veintiuno y sobre las mismas claves y en los mismos términos y bueno aquí estamos las dos últimas iniciativas se aprobaron por la cámara

y en ese sentido la enmienda de transacción no dice nada nuevo en lo que es el debate político de esta cuestión pero bueno parece que para algunos puede ser oportuno

recurrente para arremeter contra el gobierno de españa esa es la novedad que no es

yo me quedo con los planteamientos expresados por mi grupo en los dos plenos citados anteriormente y

que se debatieron en esos dos plenos y los argumentos que se planteó por nuestro portavoz en aquel caso

valen ahora igualmente que en los dos plenos que hemos citado hemos votado desde mi grupo por el cierre de la central nuclear y lo seguimos manteniendo

propuestas o con lo que son los análisis las valoraciones que hemos hecho vuelvo a decir

pero nosotros no vamos o queremos y no pretendemos y no hacer ninguna denuncia al gobierno de españa

habrá ejercido las funciones que le corresponde que entiende que le corresponden

a las que tiene derecho y en ese sentido nosotros no vamos a denunciar esa actitud bueno por eso nosotros

no podemos votar a favor del segundo punto pero sí lo haremos del resto de los puntos yo espero que

los grupos parlamentarios que firman la iniciativa pues no se opongan a que las votaciones se hagan por separado no tendría lógica lógicamente no estamos de acuerdo con las reiteradas afirmaciones realizadas por ustedes contra el gobierno de españa pero en cualquier caso

vida de la central nuclear de santa maría de garoña nos reafirmamos en los planteamientos anteriormente mantenidos en esta cámara en ese sentido hay cinco puntos en la enmienda de transacción

y así lo haremos ahora el punto número uno donde habla de los recursos pues fue votado el diecinueve del dos del dos mil quince fue votado además

porque dijo el parlamento apuesta impugnar e instar al gobierno a impugnar directamente cualquier acto ya lo votamos y lo votamos a favor y lo votaremos a favor ahora

que nosotros lo que no compartimos de la proposición no de ley pero el punto número tres sigue hablando del cierre de no autorizar una nueva licencia aludiendo a los pronunciamientos de las instituciones vascas especialmente a las alavesas también lo votamos lo votamos

en ese sentido el número cuatro igual solicitar el amparo de la unión europea lo votamos literalmente como ahora el día cinco de junio del dos mil catorce y el día diecinueve de febrero

y no cabe la menor duda de que lo mismo en relación con la participación de la comisión interinstitucional

participa la misma estamos de acuerdo ya lo hemos votado también el diecinueve de febrero así que lo que a mí me queda es decir que si ustedes son tan amables

por puntos y salvo el punto segundo votaremos a favor del resto muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

de diferentes instituciones alavesas que demuestra que este tema preocupa y mucho a la representación política alavesa por lo menos

de los grupos políticos representados decía usted señor carmelo barrio

ya se ha tenido que estamos ante las mismas circunstancias al menos en el tiempo y que no hay nada nuevo que no aportamos nada nuevo tampoco en la enmienda transada entre los diferentes grupos

en el primero de los puntos de discutir

actúe para la no apertura de un almacén nuclear y que yo sepa eso es algo nuevo porque no teníamos constancia de ello

el problema no lo sitúe usted simplemente en lo que es no es un problema temporal es un problema político ya no hablamos de temas técnicos señor maneiro es una decisión política queremos una araba sin garoña o queremos una araba con garoña con peligro para la sociedad alavesa es que ustedes dos

que siempre se hacen defensores de la ciudadanía vuelven a poner en tela de juicio los intereses de la ciudadanía alavesa y su seguridad

ya empezamos a echar de menos en sus intervenciones el señor maroto cuando

tengo una noticia que darles el partido popular votará a favor de esta propuesta se ha acabado

votará y seguirá las directrices de génova en contra de todos los intereses legítimos de la ciudadanía alavesa

pedía usted que se voten por puntos por nuestra parte

no creemos necesario que sea votada por puntos incluso pediremos que ustedes se retraten y pediremos que se retraten tal y como lo que son

hay que tomar decisiones y sobre todo hay que tomar una actitud proactiva en defensa de los intereses de araba un territorio que ustedes dicen defender y le vuelvo a repetir no lo han defendido ni lo defenderán nunca porque por encima de los intereses de los y las alavesas

los intereses de esas empresas energéticas se decía también que el cierre de garoña pasa por un cambio político en

ha sido fruto del trabajo y de la movilización popular de los alaveses y alavesas y el cierre definitivo y desmantelamiento

realizado por la sociedad alavesa y nunca porque nunca ha sido así por el cambio de color u otro pero si lo cierran bienvenido sea pero háganlo porque también habría que recordar que el partido popular ha blindado

que antes ostentaba en este caso un cargo político puesto por ciu ha sido asumida por el partido popular tienen mayoría absoluta

es decir las decisiones técnicas sobre el futuro de garoña van a estar

por personas pro nucleares con lo cual

un debate técnico estamos ante un debate político y en esos términos hay que darlo y por último invitarles a todos ustedes todos los que están aquí presentes a la manifestación que se celebrará el diecinueve de diciembre y que ha sido convocada

porque ya que todos y todas los aquí presentes somos tan coherentes en el rechazo de la energía nuclear y que queremos una araba sin garoña no pueden ustedes

lo que euskal herria bildu ha venido reivindicando siempre sin movernos de nuestro sitio coherencia y sin tener

porque lo que tenemos claro es que los intereses de la ciudadanía están muy por encima de los futuros puestos de trabajo de posibles exministros y políticos de turno

muy importante que preocupa a la sociedad y por lo tanto cabe exigir a todos los representantes políticos y a todos los portavoces que intervienen en este debate que sean francos que hablen con claridad que no utilicen la demagogia y que no sean y que por lo tanto aclaren todo lo que tiene que ver en relación a su posición política en relación a esta cuestión sin ambages de manera clara de manera meridiana cuando alguien defiende algo tiene que ser capaz de defenderlo con argumentos

posiciones políticas perfectamente respetables pero no aceptamos

trampa ni el disimulo ni la negativa de determinados representantes políticos a aclarar determinadas cuestiones que la sociedad vasca

defiende en relación a esta cuestión vamos a ver a mí me parece muy bien que defendamos todos las energías renovables

las energías renovables son un sustituto o una alternativa a la energía nuclear porque esto es falso y por lo tanto cabe decir que en el momento actual tal y como la propia consejera tapia explicó en su momento

nuclear a día de hoy es necesaria y por lo tanto no caben trampas no cabe decir que esto se soluciona con una apuesta decidida por las energías renovables porque

y me parece bien que se exijan todos los requerimientos técnicos que sean necesarios para que cualquier central nuclear pueda seguir funcionando como hacemos nosotros en nuestra enmienda de totalidad y me parece lógico y razonable

seguridad para la sociedad vitoriana alavesa y vasca es perfectamente razonable y me parece bien además y nosotros lo hemos hecho durante todos estos

entre el gobierno de españa y determinadas empresas energéticas me parece bien nosotros mismos lo hemos hecho y me parece bien que se denuncie el mercadeo existente como hoy se ha vuelto a reiterar entre el consejo de seguridad nuclear y nuclenor y me parece muy bien que se reivindique que tienen que

las voces de los diferentes representantes políticos vascos y a las propias instituciones vascas y me parece bien y nosotros mismos lo hacemos que se exija máxima información máxima transparencia máxima veracidad y cero opacidad en relación a esta cuestión me parece bien pero hay que ser valientes y hay que hablar también de la energía nuclear y de todo lo que rodea a esta cuestión porque el señor

ha venido a decir que no venimos a hablar de la energía nuclear hombre yo creo que está bastante relacionado el tema creo que está bastante relacionado el mantenimiento o no

con la energía nuclear creo que está bastante relacionado y por lo tanto aquí habría que aclarar varias cuestiones en concreto ustedes deberían aclarar varias cuestiones tanto el partido socialista como el partido popular como el partido nacionalista vasco ustedes están a favor del cierre de la central nuclear de garoña

en contra de todas las centrales nucleares que existen en españa van a proponer el cierre de todas las centrales nucleares pueden responder si quieren a esta pregunta desmantelaran cuando lleguen al gobierno si es que llegan o se mantienen

o las mantendrán y seguiremos pagando para mandar los residuos nucleares

lo que ustedes harán ustedes denuncian han denunciado y la señora rojo ha denunciado con acierto el mercadeo existente entre el consejo de seguridad nuclear y nuclenor

de seguridad nuclear van a sacar sus manos de ese consejo de seguridad nuclear o van a seguir estando dentro de él qué es lo que van a hacer van a ser coherentes

van a responder a estas cuestiones porque creo que es importante creo que upyd se moja en esta cuestión creo que alguien tiene que decir estas cosas

que por otro lado creo que son perfectamente razonables porque nosotros estamos diciendo que la central nuclear de garoña debe cerrarse definitivamente si no cumple todos los requisitos de seguridad debe cerrarse y señor

ni del consejo de seguridad nuclear pero tampoco nos fiamos de usted que además tiene más de cuarenta años por cierto no nos fiamos no nos fiamos lo que décimos es deben

todas las exigencias técnicas europeas y todas las que existan y puedan ponerse en marcha para garantizar que esta central es segura pero ya digo expliquen por favor porque no han incluido en esa transaccional la despolitización y la profesionalización del consejo de seguridad nuclear mójense toquen también esos temas no hagan únicamente propaganda para las próximas elecciones dentro de lo que es álava euskadi expliquen su posición en relación a la energía nuclear van a ser coherentes han sido coherentes en el pasado van a cerrar todas las centrales nucleares van a hacerlo van a hacerlo de verdad

si hace esto o no nosotros seguimos manteniendo

termino que se respete por lo tanto todos los requerimientos técnicos que haya transparencia

vascas de todas las decisiones que se tomen que se actúe con rigor que no se haga demagogia que no seamos hipócritas que hablemos claro

sí gracias presidenta por ser sintética para que me dé tiempo
a decir las cuatro ideas que quiero decir en primer lugar señor barrio

se trata de que ustedes que forman parte del partido popular nacional

puedan convencer a su gobierno de que cierre esa central de la que parecen ustedes que quieren cerrar y este no es un debate estético y ustedes se quieren poner de perfil votando por puntos

popular de españa sobre lo que tiene que hacerse con la central nuclear de santa maría de garoña un debate político señor barrio

y decirle al señor maneiro que también sirve para contestar al señor barrio que efectivamente las energías renovables no suplen todas las energías pero está claro que si los gobiernos no invierten en energías renovables no invierten en investigación

nunca podrán desarrollarse para poder prescindir de algo que los socialistas creemos que hay que prescindir que es la energía nuclear y le contesto quieren los socialistas todas las energías nucleares sí de forma progresiva según vayan acabando su vida útil

y la central nuclear de santa maría de garoña ha terminado su vida útil y se le quiere dar un alargamiento a su utilidad

la central de santa maría de garoña se quiere mantener por la soberbia del partido popular en españa tiene que haber energía nuclear sí o sí a pesar de sus ciudadanos

entonces pondremos un cementerio nuclear para que santa maría de garoña continúe esto ya es un pulso político que quiere mantener el partido popular

ni los ciudadanos ni los políticos ni nadie es una apuesta política que hace un partido político que en función de dónde lo debate dice unas cosas u otras y diré más

de españa absolutamente prescindible quedó demostrado con el gobierno

y por eso se planteó el cierre de la energía nuclear pero es un debate que repetimos y repetimos y que algunos se empeñan en manipular y llevar donde no es

unos tienen un modelo de energía y otros tenemos otro quienes defendemos un tipo de energía que pasa por las energías renovables

somos los socialistas y es lo que siempre hemos defendido cuando gobernamos y cuando no gobernamos y luego hay otros partidos políticos

de españa que quiere seguir defendiendo la vergüenza de las centrales que es santa maría de garoña diciendo unas cosas en euskadi porque pilla más cerca pero quienes tienen que tomar las decisiones

hoy quien gobierna y se está haciendo todo en política energética para favorecer esa situación se ahoga a los inversores de energías renovables

para acabar defendiendo algo que solo lo defienden ellos en contra de todo yo creo que no se puede hacer política a espaldas de la sociedad y en el tema de garoña

de ser flancos claros no la demagogia no la hipocresía mensajes sin ambages

ni se reabre garoña ni servirá de almacén nuclear creo que esto es claro

de gobierno que pretende gobernar españa a partir del veinte de diciembre y este es el compromiso sin engañar a los ciudadanos sin decir una cosa aquí y una cosa allí esto es lo que hay con una política energética clara con unos compromisos concretos pero lo que no se puede hacer es engañar a la ciudadanía

de forma progresiva garoña es prescindible sí uno coma treinta y cinco por ciento de la electricidad

un debate político señor barrio sí un debate estético no en política en ningún tema vale ponerse de perfil

y hay que decir qué es lo que pretende el partido popular vasco respecto a la central de santa maria de garoña por tanto el partido socialistas de euskadi hoy aquí cree que hay que votar esta enmienda en bloque

y deje de marear con el tema de garoña lo que maroto decía aquí que es lo que usted nos ha querido vender que defiende en su primera intervención no es lo que defiende el partido popular

señor maneiro una de las pocas verdades que usted ha dicho hoy es que yo tengo más de cuarenta años evidentemente

que el reactor de la central de garoña pero yo quería insistir en lo que he dicho antes es decir

usted habla de la energía nuclear en general y hoy no hemos venido a hablar si usted se lee los cinco puntos de la enmienda transaccional se dará cuenta de que hemos venido hablar

de la vejez de garoña porque tampoco hablamos de la central de garoña hablamos

cinco o diez años no estaríamos aquí hablando de ese tema simplemente la queja nuestra es porque han pasado cuarenta años porque en teoría debería de estar cerrada y porque no es que quieran prolongar la vida cuatro cinco o es que la quieren prolongar quince años más

le repito que nosotros nos fiamos mucho más del constructor que hizo el reactor nuclear que le auguró una vida útil de cuarenta años que de los parches que se hayan podido poner

nuclear nosotros no confiamos porque evidentemente pensamos que la vida económica de esa empresa ya está hecha no hay nada más que hacer quiero también repetir el anterior quiero también para que todos los palos no vayan al gobierno de madrid

una empresa no puede fiar todo su beneficio en base al peligro de decenas de miles de personas que están viviendo alrededor del lugar que se genera ese beneficio y que también la decisión no solo es

superior de energía nuclear sino también es de la empresa en cuestión yo solo repito vejez y seguridad y creo que son argumentos incuestionables contra los que no se puede presentar absolutamente

evidentemente nadie puede votar que no porque está todo clarísimo es cosa de restar desde el año setenta comienzo de la actividad hasta el veintiocho de diciembre del dos mil doce y luego sumar si hay mala suerte

en funciones del pp autoriza otra vez a que entre en funcionamiento besterik ez eskerrik asko

muchas gracias presidenta pues yo creo que es totalmente injusto

impida votar por puntos el planteamiento que ustedes presentan es totalmente injusto porque también este debate lo vuelvo a decir lo hemos tenido en otras ocasiones

ocasiones en que se ha votado por punto ha habido ocasiones en que nadie nos hemos opuesto a esas cuestiones o sea que yo creo que es

si se oponen a esa votación por puntos habría un planteamiento aquí

ya estamos acostumbrados a eso con esta cuestión

hemos sido los que hemos hecho el esfuerzo un esfuerzo que ustedes no nos agradecen

yo he dejado bien claro cuál es nuestra posición en relación con los puntos de la enmienda de transacción esto no es el pleno del congreso de los diputados no es el consejo esto no es el pleno del consejo de seguridad nuclear esto es el pleno del parlamento vasco y si hay que facilitar los acuerdos hay que facilitarlos no hay que chapotear

haciendo ustedes con este tema nosotros ya hemos hecho un planteamiento de lo que estamos dispuestos a avanzar de lo que hemos avanzado

tratar de utilizar este asunto de garoña solamente como ariete político contra el partido popular contra el gobierno no puede ser no es justo en un debate aquí en el parlamento vasco

de que son ustedes los más favorables partidarios a que siga garoña abierta para seguir chapoteando en el politiqueo chapoteando en el victimismo y que nosotros somos quienes al final vamos a ser los más interesados

su clausura en relación con los debates que ustedes de politiqueo nos plantean aquí nosotros ya hemos dicho a lo que estamos dispuestos

el punto número uno cuando habla de los recursos ya lo votamos antes es una copia es decir no hay nada nuevo en la declaración del diecinueve

recurso contra cualquier actividad decisión es decir ese tema ya lo hemos votado lo hemos votado nosotros o sea que nosotros estábamos de acuerdo con ese tema en el punto número tres el parlamento vasco insta al gobierno de españa en coherencia con los reiterados

nos tiene que permitir que votemos esto el punto número cuatro lo mismo en relación con la comisión europea transcripción de dos votaciones que hemos tenido en este parlamento la del día cinco de junio del año pasado y la del día diecinueve de febrero de este año ya lo hemos votado pues permítanos que lo volvamos a votar

el punto número cinco que es lo que afecta a las comisiones interinstitucionales e interdepartamentales bueno pues ya lo hemos votado

del gobierno de españa si hay que recurrir habrá que recurrir jurídicamente habrá que utilizar

que quepan pero denunciar lo que el gobierno de españa ejerce en derecho y fruto de sus competencias y sus capacidades eso no lo podemos denunciar

impugnarlo en todo caso pero denunciarlo no es decir en derecho también

yo la verdad es que lamento que no nos dejen votar separadamente quiero dejar bien claro cuál es nuestro posicionamiento nuestro posicionamiento en relación con esta cuestión con garoña

de febrero pasado y del cinco de junio del año pasado yo creo que esas cuestiones han quedado muy claras pero también sí que me gustaría

un día del recuerdo de

condenamos que hemos recordado en esta cámara hay una asignatura pendiente señor lópez de munain y no es una víctima de la energía nuclear es una víctima de eta se llama josé maría ryan ingeniero de la central nuclear de lemoniz asesinado por eta
que ustedes todavía no condenan el asesinato muchas gracias eskerrik asko carmelo jauna eztabaida amatuta bozketara

por desgracia ayudan a alimentar discursos xenófobos racistas e injustos eso sí las que salen perdiendo son siempre las mismas personas y las que salen ganando son también las mismas personas las que se enriquecen a costa del sufrimiento

en parís en siria en pakistán y en tantos otros lugares

y porque el tema que le planteábamos nos preocupaba y nos sigue preocupando hoy creemos que esta moción es más necesaria que nunca horregatik

momentua heldu dela compartimos el análisis del señor toña con respecto a las políticas de sensibilización es cierto no podemos cambiar la impresión

de un día para otro el mensaje tiene que ir calando

pero no hay que olvidar que de vez en cuando no viene mal que caiga un pequeño chaparrón que nos cale hasta los huesos horregatik uste dugu

a las personas migrantes que viven gracias a las ayudas sociales esas que a los demás nos quitan y que no recibimos por su culpa que no quieren trabajar pues bien parece que ese informe dice justo lo contrario cotizan a la seguridad social y pagan irpf es más económicamente más de lo que reciben ya sabemos lo que aportan pero y lo que reciben según este informe no realizan un gasto mayor que el resto de los mortales

pero eh bildu quiere ir un poco más allá no queremos quedarnos con los datos económicos o demográficos que puedan servir

nosotras y nosotros creemos que lo que las personas migrantes aportan a nuestra cultura

es mucho más nos aportan pluralidad multiculturalidad diversidad entre otras cosas y en ocasiones qué se llevan a cambio pintadas insultos amenazas

que realizan las personas migrantes en araba bizkaia

así como la contribución que realizan al crecimiento económico a la demografía y al sostenimiento del estado de bienestar eta amaitzeko

europar batasunaren oinarria da la salvaguarda de los derechos fundamentales es uno de los principios inherentes y básicos de la unión europea

de los tratados incluida la carta de los derechos fundamentales de la unión europea los convenios internacionales

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales el tratado de lisboa señala que la carta de derechos fundamentales es jurídicamente vinculante y se dispone claramente que la unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana a la igualdad

berdintasuna nuestra sociedad se caracteriza por el pluralismo

la justicia la solidaridad y la igualdad y los países occidentales de la unión europea situamos a la persona y a la dignidad humana como el centro de nuestra

printzipio hauek dira europar batasunaren oinarria esto por lo tanto es lo que encarna y representa europa

de algunos quieren destruir los valores en los que se

avanzadas como los países europeos visto como hemos visto recientemente

de parís y yo creo que hoy más que nunca tenemos que reafirmarnos en estos

la propia constitución en el título preliminar señala que españa se constituye en un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad la igualdad

desde el partido popular creemos firmemente en estos valores y que constituyen estos valores por tanto la guía de nuestra actuación política

y a los derechos humanos condenamos y hay que hacer la más firme condena de cualquier actuación

o menoscabarlos en este sentido los actos de racismo xenofobia odio constituyen claras violaciones de los derechos y libertades fundamentales

bermatzea y por todo ello los compromisos de todos tiene que ser la lucha contra la discriminación

estigmatizaciones a cualquier colectivo y garantizar la convivencia pacífica que respete la diversidad la pluralidad y la cohesión social

al impacto económico y demográfico de la población inmigrante el informe de la caixa del año dos mil once señalaba que

años anteriores había sido consecuencia directa de la llegada de estas personas

y lo que reciben y señala que el saldo es positivo en más de un cero coma cinco por ciento también la referencia

que habla de la aportación del colectivo de inmigrantes de la inmigración de las personas

y habla del incremento de esta aportación sí que me gustaría también en este debate hablar de otras ideas de otras cuestiones que hemos plasmado en nuestra enmienda que hemos presentado a esta iniciativa

provenientes de otros lugares se hayan vuelta a sus lugares de origen

que haya incidido en este colectivo y por eso creemos que es necesario actuaciones de este gobierno y dado que tiene competencias en materia de empleo en relación a este colectivo

enmienda y luego por otra parte nos parece importante resaltar la idea

respeto por las creencias y costumbres de cada uno también debe de exigirse al asunción de los valores democráticos de nuestro estado de derecho

es incompatible con recrear determinados modos de vida de los países de origen en donde sabemos que a veces en demasiadas ocasiones no se respetan los derechos fundamentales

en ese sentido hemos presentado una enmienda de transacción en la que reconocemos la aportación que realizan los ciudadanos residentes en la comunidad autónoma

de otros países y también de otras comunidades autónomas del resto de españa que como sabemos también viven y residen aquí de la misma forma que aquí hay ciudadanos que se marchan a otras comunidades autónomas y a otros sitios

hemos recogido otros dos puntos que recientemente se aprobaron en una enmienda de transacción que este partido suscribió y que nos parecen importantes que es que nos reafirmamos

respeto a los derechos humanos defendiendo un modelo de sociedad que se base en la diversidad en la solidaridad y en la cohesión social

y racista creemos importante que este gobierno

y con especial atención a aquellos aspectos que tienen que ver con la aportación a la sociedad con la interacción entre ciudadanos de distinto origen y su participación o su participación en un clima de respeto mutuo y su empleabilidad

fomentar entre la población inmigrante el respeto de los principios valores y derechos constitucionales y funcionamiento de nuestras instituciones si nos hubiera gustado que algunos puntos concretos que aportábamos

incluidos en la enmienda de transacción que se ha aprobado y que se nos ha presentado no obstante no vamos a plantear obstáculos a la aprobación de esta enmienda

que apoyamos todos los grupos con representación en esta cámara pero sí que creemos necesario y que hubiera sido necesario oportuno incidir en algunos aspectos concretos que también

egun on señorías sailburu empiezo mi intervención expresando la solidaridad del grupo socialista con la asociación de residentes africanos en vitoria gasteiz que por segunda vez han visto como aparecían en la puerta de su sede mensajes xenófobos y racistas expresamos

la preocupación ante este tipo de acciones que carecen de todo sentido y perturban la buena convivencia y dicho esto entro en el debate de la moción relativa a la aportación y vuelvo a decir a la aportación que hacen las personas inmigrantes que es lo que nos trae hasta aquí en principio quiero decir que a finales de dos mil catorce la población extranjera en la comunidad autónoma del país vasco

un seis coma cuatro por ciento de la población total siendo

y un cuarenta y nueve coma tres mujeres la distribución territorial es del diecinueve por ciento en álava

y del treinta y tres por ciento en gipuzkoa y me parece importante dar estos datos para saber

están en este momento en nuestra comunidad los datos del estudio el impacto económico y demográfico de inmigración en el país vasco elaborado

observatorio vasco de la inmigración en colaboración con el gobierno vasco y la universidad del país vasco cuantifica el impacto económico de la población inmigrante residente en euskadi

esto entra en contraposición con la persistencia de ciertas opiniones en el sentido contrario tal y como recoge el barómetro dos mil quince sobre actitudes hacia la inmigración elaborado también por ikuspegi que corrobora un importante sector de la sociedad vasca estima que las personas inmigrantes se benefician excesivamente del sistema de protección y que reciben más de lo que aportan

instalado en nuestra sociedad alentada por ciertas voces sin embargo esta percepción

y así lo revelan los estudios que se han venido realizando en los últimos años sobre los efectos económicos de las personas inmigrantes en la comunidad autónoma vasca en todos ellos los datos indican que la población inmigrante ha sido y sigue siendo beneficiosa tanto para el conjunto de la sociedad

cuando se habla de sistema de protección social se piensa por lo general en la renta de garantía de ingresos sin embargo hay que ir más allá hay que hablar de aportaciones a la seguridad social

o no es importante que esto se conozca por lo tanto si consideramos las aportaciones económicas que hacen las personas inmigrantes a través del irpf

y de las cotizaciones sociales y les restamos el gasto que hacen en servicios sociales educación sanidad y vivienda el saldo es claramente positivo tanto en dos mil ocho como en dos mil doce en ambos casos la estadística

negativamente al crecimiento económico ya que durante el periodo que abarca el estudio

gracias vuelvo a repetir a que sus aportaciones por rentas

son mucho más que el gasto en el sistema sanitario y las prestaciones para la dependencia y la educación no debemos obviar además que la crisis económica

con este colectivo por eso han ido en aumento las cuantías que reciben vía prestaciones económicas y servicios sociales si bien en todo caso el colectivo

el estudio refleja también el impacto de la población extranjera sobre la demografía vasca contribuyendo a que la población no haya disminuido en los últimos años

en la llegada de población extranjera en indicadores como la natalidad la tasa de dependencia y la tasa de envejecimiento y por último he de decir que el impacto demográfico de la inmigración que aunque no sea directamente influye de manera determinante a medio y largo plazo en aspectos relaciones con el aporte

bajo estas premisas el grupo parlamentario socialista presentó la enmienda a la totalidad a la propuesta original y sobre la base de nuestra propuesta hemos alcanzado un acuerdo transaccional con eh bildu y con el grupo nacionalistas vascos recogiendo tres puntos que consideramos básicos

defendiendo el modelo de sociedad vasca basada en la diversidad solidaridad y la cohesión social y por supuesto rechazando discursos

las personas inmigrantes a la comunidad autónoma vasca así como su contribución al crecimiento económico la demografía vasca y el sostenimiento del estado de bienestar

instaral gobierno vasco a que en colaboración con las diputaciones forales ayuntamientos y las organizaciones sociales difundan los resultados de este estudio

conozca la aportación realmente positiva que la población inmigrante supone para la sociedad vasca y evitar así falsos estereotipos eskerrik asko

edo gehienok bat gatozela ziur nago además en su intervención señora blanco reconocía estar de acuerdo con el gobierno

respecto al asunto que nos ocupa y hoy también así lo ha mencionado usted hablaba de pedagogía de que era necesario concienciar a la sociedad con datos objetivos que demostraran la aportación de los y las

y como ya le dijo el consejero toña los expertos señalan que no siempre los datos científicos y la información objetiva consiguen romper

respecto a la población inmigrante también mencionaba el consejero que no había que caer en el juego de los que pretenden mezclar siempre y en todo caso

porque a veces conseguimos precisamente el efecto contrario por lo tanto creemos que la pedagogía ha de empezar por nuestra actitud

adecuado de los tiempos en los que hablamos de determinados temas para evitar el efecto revote creo que nosotros también y nosotras como representantes

el gobierno por medio de la dirección de política familiar y desarrollo comunitario dentro de la estrategia de sensibilización tiene una línea estable de sensibilización y por eso se encargó a ikuspegi el informe sobre el impacto económico y demográfico de la inmigración extranjera en euskadi

y financió desde el gobierno vasco el informe deja meridianamente claro dando números el saldo positivo entre ingresos y gastos mejor dicho inversión imputables a los y las extranjeras tanto antes como después de la crisis los ingresos

iva vivienda cotizaciones se cifran en dos mil doce en seiscientos treinta y uno

prestaciones y servicios sociales educación sanidad vivienda supone

lo que da un saldo positivo de treinta y ocho

más de treinta y ocho millónes de euros aquí están los datos los fríos números que desmontan

a los que pretenden hacer creer a la sociedad que las personas inmigrantes vienen a vivir de las ayudas

en absoluto insistimos los datos son tozudos es positivo más de treinta y ocho millónes de superávit hacer pedagogía insisto decía usted señora blanco y a eso se dedica también el gobierno

que echan por tierra los rumores infundados sobre la población inmigrante en el foro para la integración y participación social de las personas inmigrantes se promueven políticas de sensibilización en la sociedad en la lucha

y los estereotipos contra el colectivo de inmigrantes por otro lado se ha de destacar la aportación al impacto demográfico de la población inmigrante sin la llegada de personas de nacionalidad extranjera

además de la diversidad cultural el impacto de la población inmigrante es relevante en indicadores como la tasa de natalidad

datos que encuentran su justificación en la estructura de edad de la población extranjera

evidentemente vamos a votar a favor de esta transaccional que saldrá aprobada de manera unánime compartimos lo que se dice en esta transaccional y compartimos en general

a esta cuestión compartimos también el

el impacto económico y demográfico de la inmigración en el país vasco que recientemente hemos conocido y que aporta cifras y datos ciertamente interesantes

millónes más de lo que reciben o cuando se señala acertadamente que su presencia en euskadi ha permitido sostener las cifras de población y aumentar

que el gasto per cápita en servicio de una persona extranjera es menor que el de una autóctona compartimos por lo tanto este estudio compartimos la petición que se realiza de que este estudio efectivamente se difunda y compartimos

ustedes han defendido durante sus intervenciones

quizás distinta a lo que se ha venido planteando hasta ahora o quizás no pero quiero decir algunas cosas en relación a este tema que es de extraordinaria importancia

no es xenófoba yo quiero decir que la sociedad vasca no es racista yo quiero decir que los discursos y las actitudes racistas han existido y existen pero son claramente minoritarias yo quiero decir que la sociedad vasca ha tenido históricamente un buen comportamiento y que euskadi ha sido tierra de acogida por tanto quiero poner en valor este comportamiento y evidentemente quiero poner también en valor a los propios inmigrantes y a lo importante que han sido y son para la sociedad en la que se integraron y se integran en este caso la sociedad vasca y evidentemente

todos los discursos y comportamientos racistas y xenófobos no solo por injustos sino porque además provocan el enfrentamiento entre conciudadanos y la estigmatización de determinados colectivos en ese sentido es importante lo que los representantes políticos o institucionales digamos y hagamos son importantes nuestras palabras a pesar de que es cierto que los políticos en este momento no gozamos de gran predicamento

realizar discursos xenófobos o racistas o realizar determinadas declaraciones que realizar declaraciones que vayan en la línea de favorecer la unidad y la cohesión de la sociedad no es lo mismo por lo tanto es importante atender exactamente qué es exactamente lo que décimos cuál es nuestra actitud y qué es lo que hacemos

otra cosa en relación a este tema y quiero recordar porque cabe recordarlo en este punto que en euskadi se utilizó se ha utilizado y se sigue utilizando el término español como insulto

más extremos es más se asesinó en euskadi a españoles por el simple hecho de ser españoles ni siquiera era o son inmigrantes pero en muchos casos se les asesinó por ser españoles y por no cumplir con el patrón de buen vasco que imponían eta

ese discurso y esas actuaciones que son por lo demás

deben también condenarse la pretensión de infundir miedo ante el que viene supuestamente de fuera sea lo que sea

vienen de lejos de muy lejos de décadas atrás incluso de siglos atrás maqueto es el nombre que recibieron las personas que emigraron desde otras regiones de españa a bizkaia y en general

como consecuencia del intenso proceso de industrialización que experimentaron

el término tenía evidentemente un sentido profundamente peyorativo y fue extendido por sabino arana fundador del nacionalismo vasco y del partido nacionalista vasco

que estaba sufriendo la sociedad vasca evidentemente estos discursos hay también que recordarlos y censurarlos de manera contundente

sufrimos el discurso del miedo por parte de determinados dirigentes políticos e incluso amenazas concretas contra determinados colectivos de inmigrantes hace apenas dos días la sede de la asociación de residentes afroamericanos de vitoria

xenófobos esto merece debe merecer nuestra condena más contundente

significa emigrar todos somos emigrantes o hijos de emigrantes cómo debemos recibir hoy a los emigrantes como a semejantes que nos hacen el inmenso favor de recordarnos en qué consiste nuestra humanidad

nacer es siempre llegar a un país extranjero lo que quieren quienes emigran hacia nosotros es huir de la miseria vivir en un lugar mejor del que ellos vienen los inmigrantes que llegan a nuestros países buscan aún más que sustento o la posibilidad de acceder a la ciudadanía que nosotros podemos ofrecerles puede exigirse a los inmigrantes ciertos requisitos para su integración

en primer lugar no que renuncien a todos los aspectos relevantes de su cultura de origen sino solo a aquellos que contradicen los principios constitucionales y democráticos y los derechos humanos fundamentales vigentes en el país

se suele decir que los inmigrantes tienen que asumir aceptar y respetar nuestras costumbres no es así lo que tienen que hacer es cumplir con las leyes efectivamente nos afectan a todos no tienen que comportarse del mismo modo que nosotros no tienen que aceptar lo que podemos considerar nuestras costumbres

nuestro estado de derecho y cumplir las leyes no me gusta aquello de adonde fueres haz lo que vieres me gusta más otro hecho otro dicho aquel que dice que adonde fueres cumple

vigentes es todo lo que debemos exigir a los inmigrantes es lo mismo que debemos exigirnos a nosotros mismos respetar las leyes cumplir el estado de derecho por lo demás no importa

ni la religión que se profese ni las costumbres que se tengan lo fundamental son los derechos de ciudadanía el estado de derecho el respeto escrupuloso a todos los derechos humanos el bien común el respeto a las libertades individuales y el respeto mutuo y por encima de todo no olvidar

gracias presidenta bueno el asunto que traemos ahora tiene que ver con problemáticas que en principio se tratan en esta casa de forma muy habitual pero con tratamientos

pues eso nos lleva a las políticas activas de empleo a la contratación pública

por tanto son cuestiones que en principio constituyen problemáticas de diferente naturaleza y que nosotros hoy aquí proponemos que sean tratadas como elementos constitutivos de un plan integral de rehabilitación liderado por una mesa interinstitucional e interdepartamental que en plazos breves nosotros planteamos que sea en dos meses

de dos mil dieciséis a dos mil veinte al objeto de coordinar todos los recursos disponibles en las materias afectadas la lucha contra el desempleo

algunos pírricos resultados no logra grandes avances y persisten

procedentes de ese sector que no encuentran trabajo y que llevan ya mucho tiempo en esa situación uno de estos colectivos por tanto es el de los trabajadores de la construcción que tras la crisis sobre todo en este sector

que dejó a legiones enteras fuera del mercado laboral en el debate de política general el lehendakari apuntó que ya hay programas concretos en esta materia y lo que nosotros decíamos entonces y volvemos a decir ahora es que deben de integrarse todos esos programas porque euskadi cuenta

existen a su vez graves problemas de accesibilidad y de eficiencia energética y las ayudas para enfrentar esta problemática se dispersan entre las diferentes administraciones existen por otra parte

y de otra parte las empresas del sector están pidiendo mano de obra cualificada en razón de todo ello

que incluye desde la formación de trabajadores a la incentivación de contratos de estas personas aunque el gobierno

por eso creemos necesario articular estas políticas en torno a una mesa interinstitucional e interdepartamental donde se puedan coordinar todos los recursos y que para ello se cuente con personas desempleadas que hayan sido debidamente formadas

además estas cuestiones que también fueron ampliamente debatidas con ocasión de la tramitación de la ley de vivienda y entonces los grupos compartíamos una reflexión

la posibilidad de intervenir en la mejora de la envolvente de los edificios la división de viviendas existentes todas estas cosas que se trataban a propósito de la ley de vivienda y en las que había una coincidencia

tareas es por lo que queremos inscribirlas

digamos global e integral pero que tiene que ser necesariamente liderado por una mesa interinstitucional y poner de acuerdo a todas las administraciones cómo no y por supuesto concurrencia de los agentes sociales que tienen bastante que decir en esta materia hay que tener en cuenta que más del setenta por ciento del parque edificado de vivienda existente tiene una antigüedad superior a los treinta años y por lo tanto una antigüedad superior a la primera normativa técnica por lo tanto

estos edificios están lejos de cumplir con los requisitos de eficiencia energética exigibles hoy en día de paso debemos de poner de relieve que una buena parte del consumo energético y la emisión de gases de efecto invernadero se producen precisamente en el sector residencial todo esto constituye por otra parte un nicho de empleo de indudable valor y con potencialidades evidentes

decididamente y es por esta razón que hemos presentado

iniciativa que finalmente termina siendo transaccionada con euskal herria bildu a quien le agradezco su disposición que dice

y de mantenimiento de infraestructuras con vigencia dos mil dieciséis dos mil veinte para coordinar todos los recursos disponibles en las materias afectadas el parlamento vasco insta al gobierno a que las necesidades de mano de obra derivadas de las actuaciones previstas en el plan

tras recibir la adecuada formación en nuevas técnicas y eficiencia energética

tercero el parlamento insta al gobierno a que dentro de la planificación de atención integral de las personas desempleadas de larga duración

dicha línea reunirá entre otras las siguientes características basarse en el desarrollo local y en las realidades y necesidades de las comarcas adoptar la eficiencia energética y la mejora de la accesibilidad como criterios básicos en materia de rehabilitación

por el convenio laboral sectorial del territorio como no podía ser de otra manera

señor aldaiturriaga he conocido también su enmienda y su propuesta

huye de lo que es para nosotros la parte nuclear de la propuesta

este plan integral hace falta un liderazgo fuerte efectivamente y hace falta el concurso de las administraciones que tienen competencias concurrentes en esta materia y por lo tanto veía que la enmienda que usted nos trasladaba

entendemos que ese plan de rehabilitación del que se ha hablado ya con anterioridad tiene que tener

en esta cámara de los parados de larga duración se han hecho propuestas para

pero entendemos que este sector el de la construcción que efectivamente es un sector que ha padecido como

en la construcción pero no obstante sigue siendo un sector digamos castigado y sobre todo está castigado

la parte laboral los trabajadores que han quedado sin posibilidades de tarea porque efectivamente se construye poco las inversiones

esos contingentes bueno pues efectivamente nosotros estamos de acuerdo pero claro es que todo esto no vale con una mera invocación hace falta brío hacen falta ganas y hace falta energía claro la legislatura le queda

y lo que le pedimos al gobierno es que lidere que lidere más allá de lo que es esta legislatura para el periodo dos mil dieciséis dos mil veinte esta idea de plan integral

agentes sociales para efectivamente tratar de que más allá de lo que son las políticas activas de empleo más allá de lo que sea la contratación pública crear cómo no pues en fin un ámbito donde puede dinamitarse también el trabajo porque

la lucha contra el desempleo no se va a lograr con una fórmula mágica que acabe con toda la desocupación el desempleo y el paro no

para que se pueda ir corrigiendo poco a poco esos desajustes y estas situaciones de clara injusticia social y esta es una de tantas medidas que entendemos que puede

para efectivamente atender a estos colectivos creo que es ocioso seguir hablando sobre ello espero que haya quedado entendido el planteamiento y el espíritu que anima la propuesta

salvo ustedes y bildu los demás grupos no han presentado enmiendas ignoro cuál será su posición pero bueno yo les pido

y puede ser analizado desde múltiples facetas y ramificaciones el asunto que hoy nos propone el grupo socialista contiene dos aspectos uno

y espacios urbanos en el que se coordine los recursos disponibles en la materia y otro que las necesidades de mano de obra privada de estas actuaciones

previa a la adecuada formación en tareas de rehabilitación de edificios

de vincular las políticas y medidas de fomento de la rehabilitación al impulso de la reactivación económica y del empleo algo con lo que inicialmente estamos de acuerdo

no es algo nuevo en euskadi señorías aunque hoy en día adquiera un especial protagonismo no es nuevo porque

de éxito que fue posteriormente exportado a otras latitudes administrativas inclusive fuera del estado

en los últimos años la rehabilitación ha adquirido un especial protagonismo debido a situación de crisis económica inmobiliaria y ambiental

en la actualidad supone el cinco coma nueve por ciento ha sufrido muy especialmente los efectos de la crisis de cada diez empleos destruidos tres lo han sido en la construcción

en el año dos mil ocho a sesenta y tres mil en el año dos mil trece con motivo de la crisis en euskadi se ha destruido más de treinta y cinco mil empleos directos en el sector de la construcción

es decir siete años con tasas interanuales negativas parece que el sector de la construcción este año por fin está recuperando aunque sea ligeramente

por convicción del modelo de ciudad que pretendemos una ciudad compacta poco consumidora de suelo y de materiales y de energía productora de residuos compleja y diversa cada día con más frecuencia vemos que lo económico lo social lo ambiental lo cultural la cooperación y la participación son algo indisociable en nuestras ciudades la iniciativa presentada

por cierto se habla de mantenimiento de infraestructuras y de coordinar recursos pero no sabemos a qué infraestructuras se refiere y cuáles son los recursos a que alude

pero el gobierno no puede elaborar los planes integrales de rehabilitación de todos los municipios de euskadi en primer lugar

son mayoritariamente de competencia municipal como expresamente se reconoce en la justificación de la iniciativa en segundo lugar aun cuando el gobierno actuara supletoriamente ante la inactividad municipal

y en tercer lugar porque el gobierno vasco no puede coordinar los recursos de otras administraciones

la coordinación supone la fijación de medios y sistemas de relación

en sentido propio un órgano coordina cuando adopta una decisión de obligado cumplimiento para las otras administraciones las coordinadas es decir que conlleva un cierto poder de dirección

de coordinación deben estar atribuidas por normas jurídicas de rango suficiente no pueden presumirse como ustedes lo hacen en su iniciativa y en materia de rehabilitación en euskadi no tenemos

sobre el segundo punto en que las obras de los planes de rehabilitación sean realizadas por personas desempleadas del sector de la construcción

de las cláusulas sociales en la contratación pública más que otra cosa que por cierto mañana

que no son titularidad de la comunidad autónoma no las contrata el gobierno

si las comunidades de propietarios no realizan obras no hay empresas que contratar no hay empleo tampoco la relación entre

que contrata la obra con una empresa son de naturaleza privada señorías el gobierno vasco no puede obligar a los particulares

a que contraten con empresas en las que sus relaciones laborales internas se hallan reguladas por tal o cual convenio el gobierno vasco

el plan director de vivienda y el plan renove rehabilitación por centrarnos en las más específicas sobre la materia que hoy tratamos

objetivos cuantitativos y presupuestos concretos en las aportaciones al plan de acción del dos mil quince

se dirijan a la formación de personas desempleadas orientadas a la rehabilitación sostenible

a incentivar a las personas para la contratación de esas personas a las empresas para contratar esas personas y al establecimiento de ayudas y subvenciones a comunidades de vecinos

y todas estas medidas están presupuestadas y se están cumpliendo la rehabilitación por tanto es una línea de actuación establecida en el programa de reactivación del empleo

y el desarrollo de ambos del programa y del plan se aprobó el plan renové rehabilitación dos mil trece dos mil dieciséis una herramienta dirigida al empleo en la edificación y rehabilitación sostenible

los más importantes son los siguientes el programa de ayudas a los particulares y a las comunidades de propietarios

y el programa de subvenciones a la regeneración urbana en áreas de rehabilitación integrada o en áreas residenciales degradadas entre estas últimas cabe destacar por cierto las de peñascal y corazón de maría en bilbao txomin enea en donostia txabarri en sestao o

más exitosas de este gobierno y una apuesta presupuestaria importante el importe de las ayudas a otorgar

otro ochocientos cincuenta y nueve en total uno novecientos cuarenta y nueve millónes de euros

por eso proponemos que uno de los ejes del programa del plan renove se amplíe su horizonte temporal

de modo que se potencie la rehabilitación del patrimonio edificado con el objetivo de generar empleo de proximidad

proponemos que el gobierno negocie con los agentes sociales en el seno de la mesa de diálogo social el establecimiento de medidas de formación para conseguir la cualificación profesional necesaria dirigidas a personas desempleadas con el fin de dotarlas de competencias

y entendemos que la mesa de diálogo social es el foro adecuado para tratar estos asuntos

requiere una especialización y un compromiso de las empresas del sector una mayor cualificación de las y los trabajadores es bueno tanto para la empresa porque la mantiene en el mercado como para los trabajadores a quienes dota de mayor estabilidad y mejores condiciones de trabajo

y el grupo bildu aborda difusamente estas materias y particularmente la incorporación de una contenida por bildu pero entendemos sinceramente señora zulaika

a lugares comunes como la eficiencia energética que desde luego es uno de los aspectos que se tienen en cuenta por las actuaciones

o vacías de contenido como es la llamada genérica al desarrollo local y a las necesidades de las comarcas

alcanzar una transacción con otros grupos sobre estas bases es por lo que mantenemos nuestra propuesta inicial y solicitamos el apoyo de los grupos no enmendantes eskerrik asko

y la propuesta que realiza el grupo nacionalistas vascos debo decir que ambas propuestas me parecen interesantes ambas propuestas creo que contienen buenos argumentos y ambas propuestas plantean objetivos muy loables y perfectamente defendibles es posible por lo tanto que haya empate en esta cámara

no ha sido posible en el caso de upyd vamos a abstenernos ya digo porque ambas propuestas son positivas pero en fin seguramente

y no nos gustaría votar en contra de ninguna de ellas para la siguiente ocasión hay dos opciones que se cuente con upyd aunque en este caso es cierto que no hemos presentado enmienda

es importante ciertamente que lleguen ustedes a una transaccional o que planteen
mejores argumentos para convencer a un servidor gracias eskerrik asko maneiro jauna